gracias señora presidenta buenos días a todos en desarrollo de nuestra constitución

corresponde a las instituciones del país vasco en la forma que se determina en dicho estatuto el régimen de policía autónoma

de nuestro territorio y a través del mandato que establece la disposición transitoria cuarta del propio estatuto corresponde a la junta de seguridad establecer

no fue hasta el año mil novecientos noventa y dos cuando se aprobó la primera ley de policía del país vasco que pretendía aglutinar y poner fin a la dispersión normativa

una mayor seguridad jurídica y aglutinara en un mismo texto legal los derechos y obligaciones del cuerpo sí que me gustaría aprovechar la ocasión y hacer una especial mención a todos los profesionales que contribuyeron a la consolidación de este cuerpo

sobre el modo y las condiciones en las que se debía de poner en funcionamiento motivado por la carencia de un marco normativo adecuado y que dentro de un marco político y social muy delicado cumplieron con la tarea de garantizar la seguridad del conjunto de los vascos los miles de hombres y mujeres que conforman el cuerpo policial de la ertzaintza han cumplido con creces la labor encomendada por las instituciones vascas en aras

la profesionalidad del conjunto de agentes que conforman la ertzaintza también ha quedado patente durante los largos años de lucha contra el terrorismo de eta

realizar un merecido reconocimiento a su labor y un recuerdo

las víctimas de este cuerpo el decreto trescientos quince barra mil novecientos noventa y cuatro modificado por el decreto treinta y seis del dos mil cuatro

de la policía del país vasco establece entre otras cuestiones las reglas básicas y comunes para el ingreso en las escalas y categorías así como los requisitos para el acceso a los procesos selectivos de ingreso por turno libre en los cuerpos que integran la policía del país vasco

la carta de los derechos fundamentales de la unión europea en su artículo veintiuno incorpora la edad entre los supuestos

la constitución española indica en su artículo veintitrés que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos en su artículo ciento tres expresa que el estatuto de los funcionarios públicos regulará el acceso a la función pública de acuerdo

la ley sesenta y dos barra dos mil tres de medidas fiscales administrativas y de orden social en su artículo veintiocho define el principio de igualdad de trato como la ausencia de discriminación directa o indirecta incluyendo entre los supuestos el de la edad y por último el artículo catorce de nuestra carta magna proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia la edad no es una de las circunstancias recogidas expresamente

pero en ello no ha de verse una intención tipificadora cerrada y excluyente respecto a cualquier otra de las precisadas en este texto legal

otra circunstancia personal o social cuestión extrapolable por tanto a la edad por ello la edad

es una de las circunstancias comprendidas en los artículos catorce y veintitrés de la constitución desde una perspectiva excluyente de criterios discriminatorios

tiene las puertas abiertas a la función pública con independencia de su edad ya que la edad es un elemento diferenciador y por tanto el legislador puede fijar objetivamente

esto es cierto pero siempre que sean objetivos y razonables para el buen desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo

evitando privilegios y desigualdades discriminatorias entre aquellos siempre que se encuentren en situaciones de hecho que requieran un tratamiento jurídico similar ante estas situaciones la legislación debe ser idéntica para el conjunto de los ciudadanos

encontraríamos ante un tratamiento diferenciado derivado de una conducta arbitraria o cuando menos indebidamente justificada del poder legislativo

por su mismo contenido una decisión diferente pero para cumplimentar dicha finalidad resulta indispensable huir de decisiones

por tanto justificaciones objetivas y razonables conforme a los criterios que deban aplicarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida planteada

tratando de evitar exigencias irrazonadas por lo tanto ese derecho a la igualdad recogido en el artículo primero de la carta magna garantiza también en el acceso a la función pública o a lo largo de la evaluación funcionarial

ello no impide como he citado anteriormente que el legislador no pueda establecer reservas de ley criterios y exigencias diferenciados de acuerdo

las necesarias capacitaciones exigibles para el desempeño de las funciones del puesto a desarrollar

de las labores propias de la policía la exigencia de un límite de edad para el acceso en esta caso a la ertzaintza se ajusta a criterios objetivos

tal y como lo han venido estableciendo los tribunales de justicia es evidente

que el acceso con una edad superior a los treinta y cinco años impida un adecuado desempeño de las funciones policiales es cierto

son eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas e incluso penosas lo que requiere sin duda determinadas aptitudes

con una edad superior a los treinta y cinco años no pueda acreditar esas condiciones físicas y psíquicas aptas para el desempeño de sus funciones

a la hora de acreditar unas adecuadas condiciones psicofísicas son su mera voluntad individual su actitud y su empeño a la hora de mantener una óptima preparación

profesionales consideramos en armonía con las resoluciones judiciales de los tribunales de justicia que el establecer un límite de edad para el acceso a la ertzaintza ni es razonable

ni es proporcional al fin perseguido la edad no puede establecerse como veto como el único veto para poder ser aspirante a formar parte del cuerpo de la ertzaintza

de los aspirantes no podemos establecer apriorismos y prejuicios infundados y no demostrados que limiten el acceso

cuando incumbe a la administración la exclusiva responsabilidad de demostrar la existencia de razones objetivas que justifiquen la diferencia de trato como es el caso de fijar un límite de edad para el acceso al cuerpo de la policía autonómica no existe razón objetiva alguna que nos haga sospechar que una personas con treinta y seis cuarenta o cuarenta y cinco años no pueda superar las pruebas psicofísicas exigidas para acceder a la ertzaintza

para realizar un razonamiento anticipado que concluya que una persona dentro del cuerpo con una edad muy superior a los treinta y cinco años pueda desempeñar adecuadamente las labores propias de la función policial y por el contrario

una edad inferior a los treinta y cinco para acceder a dicho cuerpo no tiene sentido que el paso a la segunda actividad para los agentes esté fijado en los cincuenta y seis años y la exigencia de la edad máxima para poder acceder sean los treinta y cinco

nosotros creemos que no se debe de exigir la partida de nacimiento

son miles los vascos y vascas que podrían beneficiarse

supone una verdadera fuente de desigualdad por tanto

vetos cronológicos ni impongamos trabas temporales dejemos que sean las capacidades las que decidan dejemos que sean las aptitudes las que expresen

permitamos que las limitaciones propias sean las que limiten y que los méritos las virtudes y las cualidades sean las que decidan e impongan su ley por ello les pido
el voto favorable a nuestra propuesta nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

más que por el contenido por el proponente es una iniciativa que dice textualmente el parlamento vasco insta al gobierno

entre los requisitos para poder opositar a cualquiera de los cuerpos policiales de la comunidad

y decía que sorprende por quién la propone porque el partido popular propone esta

estamentos en el estado en otras oposiciones para otros cuerpos como la guardia civil por ejemplo se mantiene los límites de edad en treinta años pero todavía ayer recogía en una página web una de las que hacen cursos para

se dice que el requisito es tener cumplidos los dieciocho años de edad antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes

dentro del año en que se publique la correspondiente convocatoria de treinta años bien por eso decía lo de la sorpresa

la verdad es que cuando ante una oferta pública de empleo hay un límite en este caso el de la edad la primera pulsión

por qué esta limitación de edad

no supondrá una limitación no supondrá una vejación o una dejación de la igualdad no ira contra la igualdad de oportunidades pues esta es una pregunta que nos hacemos y una pregunta que aunque el desarrollo al límite de esa reflexión nos lleve a que podría darse la circunstancia

y pasar directamente a la segunda actividad

esperando la edad legal de jubilación entonces yo creo que esto sería en sí una contradicción

al contenido es cierto que la sentencia

a la imposición de un límite de edad en el cuerpo de policía se lee textualmente

es que no sea otra que la establecida para la jubilación forzosa y si bien es posible establecer otras inferiores por ley en cuanto excepciones ciertamente

aunque ese es un juicio de constitucionalidad que en su caso corresponderá a hacer al tribunal constitucional cuando se le plantee por los cauces previstos luego

la limitación de edad que se pone que se ha venido poniendo en todas las ope

tiene basamento normativo legal que tiene dos soportes uno es el decreto trescientos quince barra mil novecientos noventa y cuatro de diecinueve de junio

que aprueba el reglamento de selección y formación y que este fija la edad para el ingreso en la ertzaintza en treinta años para el ingreso en la categoría de agentes y cuarenta como máximo

decreto establecen como la señora llanos se ha referido en treinta y cinco y cuarenta y cinco años respectivamente

tiene otra base tiene otra base legal como es la ley

en cuya disposición adicional octava se dice textualmente el gobierno vasco determinará reglamentariamente

la policía del país vasco así como los requisitos de edad y estatura que resulten exigibles esto es la base para que

se pueda poner desde nuestro punto de vista el límite

en la sentencia del tribunal constitucional treinta y siete barra dos mil cuatro

que introduce la diferenciación de trato por razón de la edad como circunstancia objetiva en el acceso a las funciones públicas dependerá de cada supuesto en particular

en los supuestos en los que no exista para tal diferenciación de trata justificación razonable es decir con este contexto

conveniente es que la base de una disposición adicional en una posible en una futura reforma de la ley de policía vasca se incorporará este requisito este requisito como establece la sentencia del tribunal constitucional es decir que se incorporará

de manera más específica a que se lograra una habilitación específica

por lo tanto nosotros no le vemos desde el punto de vista legal ninguna

a que se ponga en las opes

la limitación de edad a los treinta y cinco y cuarenta y cinco años no le encontramos ninguna justificación

creemos que hay suficiente base legal y normativa en la que apoyarse para mantener disposición de todas formas para nosotros sin obviar el principio de igualdad que consideramos insisto está salvaguardado por las normativas en las que

la ley de policía vasca y el decreto de selección y formación de la ertzaintza

uno es el rejuvenecimiento necesaria que debe haber en la ertzaintza y esto me dirá señora llanos que

conseguirlo si no le ponemos límite de edad y en cualquier caso

lo fundamental lo más importante es que

efectivos pactados entre gobierno vasco y el gobierno central y esto desde nuestro punto de vista

como haría de salir aprobada su

haría que se retrasará la ope y desde nuestro punto de vista estaría yendo contra un principio que para nosotros es muy importante como es

por nuevos efectivos por nuevas incorporaciones que solo se pueden realizar a través de las ofertas públicas de empleo por lo tanto nosotros

a votar lógicamente nuestra enmienda que por razones

ser transaccionada con el equipo con el grupo que al gobierno pero que en cualquier caso consideramos que el gobierno se manifestará

de nuestra posición porque al fin y al cabo lo que estamos creo de acuerdo tanto el gobierno como nosotros es en que mantengamos el nivel de los ocho mil efectivos

como referente en la ertzantza y por lo tanto ya no ha sido posible porque el grupo nacionalista no había enmendado la proposición no de ley del grupo popular entendemos que

en que lo importante en este caso para nosotros es que salga adelante la ope cuanto antes puedan incorporarse nuevos efectivos a la ertzaintza y que a lo largo de esta legislatura y en el futuro

sea un referente que se consigue que se plasme efectivamente muchas gracias

creo que el partido popular tiene razón creo que la señora llanos tiene razón tanto en los argumentos planteados en la justificación de esta iniciativa como en los que ha expuesto desde esta tribuna por eso no presentamos enmienda en su momento y por eso

de acuerdo con que debemos instar al gobierno a eliminar el límite máximo de edad entre los requisitos para poder opositar a cualquiera de los cuerpos policiales de euskadi

al menos de momento ningún otro grupo ha rebatido

argumentos y estos planteamientos que entendemos han sido bastante claros y bastante contundentes sabemos loque dice el artículo catorce de la constitución española los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento

sabemos lo que dice el artículo veintiuno punto uno de no discriminación

se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo raza color orígenes étnicos o sociales características genéticas lengua religión o convicciones opiniones políticas o de cualquier otro tipo pertenencia a una minoría nacional patrimonio nacimiento discapacidad u orientación sexual además y tal como se dice la justificación de la iniciativa han sido varios los pronunciamientos de los tribunales respecto a que la edad no puede ser utilizada

a la función pública la sentencia del tribunal supremo del veintiuno de marzo de dos mil once que anuló el acuerdo del consejo de ministros de trece de junio de dos mil ocho

de la dirección general de la policía y de la guardia civil es también meridianamente clara reconoce el derecho del recurrente a no ser excluido por ese motivo la edad

y declara nulo el límite de edad establecido en el real decreto por el que se aprueba el reglamento de los procesos selectivos y de formación en el cuerpo nacional de policía

establecidos en distintas comunidades autónomas y ciudades españolas sevilla barcelona huesca cádiz o la propia comunidad valenciana

pedimos el ararteko respondía a un ciudadano afectado que debo reseñalarle que coincidimos con usted en que los pronunciamientos judiciales que se vienen produciendo con respecto a los límites de edad fijados para el acceso a los distintos cuerpos policiales deberían llevar a reconsiderar la regulación existente

lo que en nuestra opinión es claramente una discriminación inaceptable que queremos se corrija cuanto antes no hay límites de edad ni en los estados unidos ni en reino unido ni en israel ni en suecia ni en dinamarca ni en otros países el parlamento catalán aprobó

el límite de edad para el acceso a los cuerpos de bomberos y de policía por la misma razón discriminación

parecida ha ocurrido en otras partes de españa y seguramente sigan ocurriendo según por lo tanto la legislación vigente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto no podemos ser discriminados por razón de sexo raza condición social o edad

lo suficientemente claras como para que no pueda haber demasiadas dudas en esta cuestión

en nuestra opinión habría que valorar objetivamente como se ha dicho las cualidades y las facultades

no su edad siguiendo criterios de mérito y capacidad en fin es lo que nosotros pedimos al apoyar esta moción del partido popular la necesidad

que el portavoz socialista ha planteado par justificar esta discriminación

y además entendemos que es incidir en la propia discriminación por lo tanto y ante la inminente convocatoria por parte del departamento de seguridad de

y las diferentes convocatorias que ayuntamientos preparan para cubrir puestos de policías locales apoyamos lo que el partido popular nos ha traído instar al gobierno vasco a eliminar el límite de edad entre los requisitos para poder opositar

para tratar sobre un tema muy concreto como era la pnl presentada por el grupo popular relativa a eliminar el límite máximo de edad para presentarse a las pruebas de acceso

y nuestro planteamiento era claro como luego explicaremos era contrario a esta propuesta y por ello entendíamos que no había lugar a presentar enmienda de totalidad al respecto de esta cuestión concreta y urgente

al conocer de las enmiendas de totalidad presentadas por el grupo socialista y eh bildu cuyo contenido poco tiene que ver con la propuesta inicial y urgente presentada por el grupo popular

y eh bildu llevándolo nuevamente al tema del modelo judicial tratando de reproducir el debate

visto esto solo había faltado que nuestro grupo hubiesemos presentado una enmienda de totalidad aprovechando

y su adecuación a sus funciones estatutarias por las duplicidades e ineficacias generadas como pone de manifiesto el reciente informe sobre análisis funcionamiento institucional

ya teníamos para hoy un totum revolútum y además por la vía de urgencia pero no nosotros nos centraremos en el debate planteado con urgencia por el grupo popular no rehusando tampoco los otros debates planteados pero cada tema en su momento y entendemos que en este punto no es el momento

previamente diremos que nos sorprende el planteamiento del grupo popular

que ahora introduce este tema y por urgencia ante la proximidad de la convocatoria de la promoción número veinticuatro de la ertzaintza no habiendo habido recientemente ninguna novedad significativa al respecto hablan en la justificación

y apela a varios pronunciamientos de los tribunales y en base a todo ello solicita la eliminación del límite máximo de edad a este respecto hemos de decir

variaciones respecto a la edad establecida inicialmente fueron treinta años posteriormente se incrementó a treinta y dos y en el dos mil diez con el gobierno socialista se elevó a treinta y cinco años y se ha aplicado en todas las promociones en las veintitrés promociones hasta hoy convocadas

como también se manifestaba por el señor unzalu hay razones legales para mantener este límite de edad no son las bases de convocatoria las que imponen dicho requisito como pudiera ocurrir en otros casos en los cuales sí que ha habido pronunciamientos judiciales al respecto

y así procede del mandato de la ley de policía vasca de mil novecientos noventa y dos aprobado por esta cámara

que aprueba el reglamento de selección y formación de la policía del país vasco y

y esta normativa afecta tanto a la ertzaintza como a los policías locales y su posible modificación tendría que ser aprobada tanto por el consejo de la ertzaintza

conllevaría evidentemente un retraso injustificado para la nueva convocatoria e inminente convocatoria que creo que casi nadie de los aquí presentes pretenda incluso a nivel legal el proyecto de ley de la cuarta modificación de la ley de policía vasca iniciado por el gobierno socialista elevaba

y en cuanto a las alegaciones a esa propuesta únicamente hubo alegaciones de eudel en el sentido que planteaba rebajar el límite de edad a treinta años en la policía local argumentando que mejoraría la calidad de la policía local el sindicato profesional de la ertzaintza que planteaba que la edad máxima se determinase reglamentariamente y no por ley en cuanto a operatividad para una posterior modificación y la asociación de jefes de policía local de euskadi

el ascenso en la edad máxima exigida a los treinta y cinco años también hay

relativos a que la edad no puede ser utilizada como límite para poder presentarse a pruebas de acceso

no puede establecerse un límite de edad máximo y es cierto que

que en nuestro caso la legitimidad y proporcionalidad de tal requisito ha sido validado por las sentencias del tribunal superior de justicia del país vasco

y dieciséis de septiembre de dos mil nueve y en dichas sentencias se apela también al artículo seis de la directiva comunitaria dos mil barra setenta y ocho

que hace referencia y considera que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente por una finalidad legítima

y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios y entre las diferencias de trato

que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un periodo de actividad razonable previo a su jubilación también se han mencionado aquí alguna sentencia del tribunal constitucional

y otra de tres de agosto del ochenta y tres que establecen que la edad es legítima como elemento diferenciador por tanto como ve

y muy claros que avalan este límite de edad también hay argumentos o razones psicofísicas operativas y de eficacia policial que justifican y así se reconoce

unas condiciones físicas apropiadas a la naturaleza de las funciones encomendadas a la escala básica

en aras a mantener una estabilidad de la plantilla y lograr la mayor eficacia policial aprovechando los mejores años de los policías teniendo en cuenta que irremediablemente la pérdida de tales condiciones con la edad es inherente a la condición humana tenemos que ser conscientes que las tareas fundamentales de la profesión policial

y además existen una serie de factores que inciden con mayor fuerza en el deterioro físico de los policías tales como su peligrosidad y penosidad y

y por encima de los cincuenta y cinco años de edad la capacidad funcional de un policía

por tanto no se trata de un problema de hallarse o no en las adecuadas condiciones en el momento de ingreso lo que desde luego es exigible y a ello responde las pruebas físicas y otras exigidas en la convocatoria sino de la garantía de estabilidad de la plantilla ingresada

a la administración estabilidad porque indudablemente ello contribuye al logro de la necesaria eficacia del cuerpo policial en su conjunto

confluye además ya que se ha mencionado aquí una dificultad añadida que es su elevada pirámide de edad

que se concentró en apenas una década lo que en la actualidad obliga a una renovación con personal más joven para estabilizar progresivamente la plantilla durante los próximos años la edad media de los miembros de la ertzaintza a fecha uno de octubre de dos mil trece es de cuarenta y cinco coma ochenta y uno años por tanto solo podrá evitarse mediante una planificación

progresivo y a este respecto creo que lo comparte la señora llanos

haciendo referencia al acta decía que es necesario un rejuvenecimiento de la plantilla y que tengamos una plantilla rejuvenecida porque como se ha dicho aquí tiene más de treinta años y empieza a ser una media de edad elevada esto creo que son unas razones objetivas además compartidas por usted

y las condiciones físicas son elementos esenciales para la función policial por su eficacia operatividad riesgo y penosidad

el límite de edad señalado los treinta y cinco años guarda la necesaria proporcionalidad si tenemos en cuenta que el ingreso puede hacerse desde los dieciocho años

me refería anteriormente o hasta el cumplimiento de una determinada edad

la edad fijada resulta también una limitación proporcionada si tenemos en cuenta los límites de edad que son habituales para las convocatorias de plazas de las policías europeas aquí se hacía referencia antes a policías más lejanas

la guardia civil el límite máximo de edad es de treinta años las fuerzas armadas el límite máximo de acceso son veintinueve años y hay una sentencia del tribunal supremo sala de lo contencioso referente a las fuerzas armadas que le recomiendo que

creo que también es exigible una coherencia y en este caso lo coherente sería instar al ministerio de interior al ministerio de defensa para que también eliminen esos límites máximos de edad de acceso a la guardia civil y a las fuerzas armadas en ese caso los mossos desquadra treinta y cinco años la policía foral de navarra treinta y seis la policía nacional francesa treinta y cinco la policía irlandesa treinta y cinco y los carabinieri de italia treinta y dos

los menores dejando al margen el importante aspecto de que el coste económico y el tiempo necesario para su formación hacen conveniente para la sociedad que la carrera profesional de un ertzaintza sea lo más amplia posible

contenido en la disposición adicional cuarenta y siete de la ley general de seguridad social

que garantiza el adelanto de la edad de jubilación para el conjunto del cuerpo y que atiende precisamente a la existencia de una edad máxima de acceso al cuerpo

de esta edad máxima supondría potencialmente el desequilibrio en el cálculo de la cotización reforzada

para hacer una referencia a las otras enmiendas respecto a la enmienda planteada por el

como decía essimilar a la planteada en el debate del veinticinco de abril y que también en aquel debate nuestro grupo manifestaba que

el compromiso de tomar medidas necesarias para conseguir mejorar la ertzantza como servicio público esencial y como policía integral y dentro de eso estaba también

agentes o el número que de acuerdo con la junta de seguridad fuese necesario para mantener y garantizar este servicio público

no hemos presentado enmienda de totalidad porque el tema lo veíamos muy concreto y muy circunscrito al límite máximo de edad y tal y como está planteada

y respecto a lo planteado por eh bildu en su enmienda

reiterarme en el debate mantenido el veinticinco de abril de las manifestaciones del señor iturrate eskerrik asko eskerrik asko

tan concreta ya da usted vueltas para decir que no bien a upyd

de las justificaciones que él ha dado y completaban las que yo había dado en mi primera intervención

ya hemos debatido en muchas ocasiones creo que usted y perdóneme por la referencia a españa que le voy a hacer

evidentemente siempre tiene que hablar de la cantidad de policía que existe pero habla

le sobra toda la policía es más y si acaso existiese alguna

una policía de escaparate que evidentemente mirase para otro lado hacia determinadas actitudes esas que usted califica de intrascendentes o insignificantes

mirase para otro lado esa es la clase es su modelo policial y

que desde luego nosotros no compartimos en absoluto con relación a las justificaciones dadas por el partido socialista y partido nacionalista vasco

no sé si la sentencia lo que hacía era clarificar por qué era una desigualdad se la tendrá que leer usted porque yo lo tengo muy claro

es una discriminación en el caso de la guardia civil

del ejército se dan cuestiones de la carrera militar son las que se están dando para eliminar pero en el caso de la policía nacional no la policía nacional ya ha eliminado la edad

el grupo popular en el que en el año dos mil nueve empezó ya a solicitar un incremento de la edad

el que dijo que no yo creo que hablo de

pero el rejuvenecimiento tendría que venir por datos objetivos pongamos unas aptitudes físicas

el rejuvenecimiento no lo puede dar la edad pero es que la razón no es esa y ustedes lo saben y se ha dado aquí

alguien en la policía que esté ya cercano a su jubilación pues igual que en otros puestos de función pública

que una persona de cincuenta y cinco años que se presente a cualquier otro puesto de función pública no puede ser admitida

y no se va a poder amortizar su plaza entonces no

tenemos que tenemos amortizar eso pongamos veto en el resto de los accesos a la función pública

pongamos una edad en la que permita amortizar y usted habla de rejuvenecimiento oiga mire que porque hay que compensar lo ha dicho al señor zorrilla la plantilla

pongan ustedes veinticinco años ya verá como de golpe se rejuvenece y la edad media de la plantilla baja pero creo que no es algo lógico

ese planteamiento en su momento en el congreso sino que aquí en la cuarta modificación de la ley de policía nosotros solicitábamos una enmienda

que con el representante del partido nacionalista vasco entonces para la hora de transar enmiendas yo hablé y se mostraba bastante proclive

a que llegáramos a una transacción y admitirla qué ocurre que entonces ustedes estaban en la oposición y ahora están en el gobierno y las cosas cambian mucho las cosas cambian mucho pero ya le digo nosotros propusimos esa

que la cuarta ley de policía la cuarta modificación de la ley de policía no se llevó a cabo y no se llevó a cabo entre otras cosas porque no interesaba porque además

y que bueno pues si al final eso quedaba dilatado en el tiempo pues pasó lo que pasó que a pesar de que nosotros solicitamos que el mes de julio se habilitase

ir adelantando esa modificación de la ley de policía finalmente no se pudo llevar a cabo se disolvió esta cámara se convocaron las elecciones y esa ley no vio la luz eso sí otras que su tramitación se había iniciado más o menos parejas esas sí vieron

y es por las implicaciones económicas ya le digo que tienen dicen que hombre que no que las sentencias judiciales que tampoco

que no le ven pegas legales pues hombre dos sentencias judiciales una que a la junta de andalucía

por vetar a mayores de treinta y cinco en acceso a la policía y otro que el tribunal supremo anulaba el límite de la edad si usted considera que eso no son pegas legales

yo sí quiero un pronunciamiento del señor zorrilla si con

como previsiblemente parece se va a vetar a los mayores de treinta y cinco años y al final

eso qué significa que a partir de ese momento y para futuras convocatorias se eliminará definitivamente el veto

iniciar ese trámite judicial creo que sería bastante más

sí señora llanos desde la legitimidad que me da ser portavoz en este momento de un grupo que dijo lo mismo cuando estaba en el gobierno y cuando está en la oposición y una aclaración cuando yo

de lo que usted propone no he dicho que alguien podría estar que no se amortizara su plaza porque le quedaban pocos años para la jubilación

que yo le planteaba es que si se cumple estrictamente lo que usted dice

tendrán ya la edad de pasar a la segunda actividad es decir que no van a desarrollar la función profesional

a la que han accedido eso es lo que yo quería comentar y usted rejuvenecimiento no es cuestión de la edad pues dígame de qué es

si no es en que entren promociones más jóvenes que hagan que la media de edad bajen

en la guardia civil no se hace esto por no sé qué de la carrera militar yo no entiendo no entiendo ni de militares ni de guardia civiles pero es que alguien entra a la guardia civil siendo teniente yo entiendo que cuando se limita la entrada es porque entran de guardias rasos o como se diga

claro tienen que empezar desde el principio de guardia para luego ser cabos me imagino sargentos etcétera porque yo no he visto a nadie que de repente

yo entiendo y al señor maneiro y a usted le diría que bueno sobre esto hay bastante

yo le he presentado antes y le he leído sentencias del tribunal constitucional que pueden amparar perfectamente poner límites de edad cuando estas son específicas y yo le he dicho en estos momentos

y del decreto de selección y formación y le he dicho más es una

de la ley de policía que sería conveniente en el momento de su reforma afianzarla tal y como dice la sentencia del tribunal constitucional haciendo una referencia expresa

no la del tribunal supremo la del tribunal constitucional bien en cualquier caso le diré tanto a usted como al señor maneiro que esto de las edades es aleatorio para muchas cosas

por qué a los sesenta y cinco ustedes ya han ampliado se amplía hasta

para unos a los setenta por qué se vota a los dieciocho años y no a los dieciséis imponemos en más de una

en más de una actividad se pone un límite de edad aleatorio porque se considera que a los sesenta y cinco años una persona ya debe jubilarse

o por qué los mineros se pueden jubilar con cuarenta y tantos años por lo tanto

pero yo entiendo que de por sí de por sí los límites de edad no son discriminatorios son aleatorios en función de una actividad que se va a desarrollar eso es lo que yo entiendo de momento con lo que hay y señor zorrilla vamos a ver

va directamente contra la ope ya en vías de convocatoria por el departamento de interior

se me está creando una sensación de tener que decir lo que dice el grupo del gobierno porque esto señor cuando yo digo de los ocho mil es porque quiero que se haga la ope

después del proceso de selección lo hagan cuanto antes y esto esta iniciativa como otras son dilatorias van a ir en contra directamente de esa ope y yo lo que quiero

que no se pueden mantener de otra manera si no es convocando opes convocando opes que no tengan cortapisas que se hagan porque

que ahora para modificar si esto saliera adelante la propuesta que nos hace

sería hacer todas las modificaciones normativas que retrasarían

esta convocatoria y la resolución

del grupo que apoya al gobierno porque coincidimos con él en que se mantengan los ocho mil efectivos como referente e insisto

de totalidad que hoy está sobre la mesa pero eso no se puede hacer más que con

hacer el departamento de seguridad muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

es el de la dispersión legal el de la incoherencia competencial

en su vertiente cuantitativa y por eso creo que además

recursos actuales coherente además e integrador de país

aclarar ese caos lo que demandábamos con nuestra enmienda antes de lanzarnos a otras carreras

y por eso considerábamos además por que era un previo a cualquier otra consideración porque todo lo demás

parches no enfrentar el problema consideramos que es dejar precisamente que se enquiste una última mención señora llanos perdone

tal y como se emplea en ceuta parece ciertamente proactivo eskerrik asko

eskerrik asko decía la señora llanos que para ser concreto bueno

decía que no se habían dado aquí argumentos para rebatir los planteado por la señora llanos creo que hemos dado

razones o argumentos psicofísicos operativos y de eficacia policial razones o argumentos comparativos con otras policías europeas y razones o argumentos económicos me instaba también

me refería que hace referencia

y en este caso yo la he leído y es bastante clara en el sentido de que no supone el límite de edad ninguna discriminación
constitucional isiltasuna mesedez también hablaba de la sentencia del tribunal superior de justicia de andalucía en el cual declaraba

convocatoria de la junta de andalucía para policías locales pero como le decía antes al principio los casos son distintos los casos son distintos y en aquel caso en el decreto de la junta de andalucía

a las plazas de la policía municipal fuera un límite razonable

tenemos dos sentencias aquí en euskadi del tribunal superior de justicia del país vasco sobre dos recursos interpuestos contra convocatorias

una de seis de octubre de dos mil ocho y otra de dieciséis de septiembre del dos mil nueve

deja meridianamente claro cuál es la legalidad del límite que se establece en el decreto de formación y acceso

decía que la policía nacional ha eliminado la edad gracias a ustedes bueno yo le recuerdo

supremo que anulaba el límite en concreto en la escala ejecutiva y fruto de esa anulación de la escala ejecutiva incluso alegaba para justificar

ilegalidad ese límite el no establecimiento de límite

y sí que en la escala ejecutiva se eliminaba ese límite que se establecía para la policía nacional lo que ocurre es que luego se hizo tabla rasa y se suprimió o se eliminó el artículo siete

se ponga veinticinco años bueno creo que antes hemos mencionado que lo que se trata es de establecer

inicialmente treinta luego treinta y dos y luego treinta y cinco guarda entendemos la necesaria proporcionalidad repito como hemos dicho antes que desde los dieciocho años se puede acceder ya a las pruebas para ser miembro de la ertzaintza respecto a bildu

me decía que quién era yo para decidir o para manifestar si el tema se debía tratar en este punto o no

nuestro parecer es que hay otros momentos y ha habido y habrá

y en este caso nosotros nos íbamos a ceñir en el tema planteado

urgente ante la inminente convocatoria de la vigesimocuarta promoción de la ertzaintza bueno respecto al señor unzalu

repetirle lo que ya hemos manifestado y lo que le he comentado personalmente que nosotros hemos presentado enmienda de totalidad por los argumentos que le decía porque

o sí o no y en ese caso no nos da margen para llegar a una enmienda transaccional con usted y aun repitiendo lo que decía antes de que desde nuestro grupo y desde el departamento se comparte su preocupación y su interés en que los agentes bueno y de su grupo y de todos

tal y como está redactada que en todo caso antes de finalizar la presente legislatura

bastantes problemas a la hora de sacar las distintas convocatorias que se intentaron en concreto dos y dentro de las dificultades dentro

y dentro de que la situación económica lo permita es voluntad

para convocar no una sino varias convocatorias para conseguir que los agentes sean los necesarios para cumplir un servicio público esencial como es

buenos días señorías la moción que trae hoy el grupo parlamentario socialista

que el trece de diciembre le formulábamos al señor consejero de empleo vivienda y políticas sociales a quién ya de paso y aprovechando esta ocasión le enviamos un caluroso saludo y el deseo de una pronta recuperación decíamos le interpelábamos al señor consejero sobre

habilitar el registro para inscribir y calificar a los centros especiales de empleo

que haga una pequeña reseña de lo que son los centros especiales de empleo la ley de integración social de los

en el artículo cuarenta y dos define a los centros especiales de empleo como aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad

el reglamento de los centros especiales de empleo plantea que

que tengan competencia para ellos serán estas las habilitadas para llevar a cabo este trabajo este servicio el señor consejero nos contestaba entonces

teniendo en cuenta que hay solicitudes planteadas para poder inscribirse como centros especiales de empleo no entendíamos esa demora

por otra parte el real decreto

en materia de políticas activas de empleo se dice que en materia de fomento y apoyo de empleo se traspasan todas las funciones en materia en relación con los

que la habilitación para esto descansa sobre nuestra administración y sin embargo pues esto a día de hoy todavía sigue sin hacerse

qué es lo que ocurre con este asunto pues que efectivamente

y no hemos habilitado ese registro lo cual llama la atención porque debatimos con frecuencia sobre políticas de empleo los planes discutimos hasta la saciedad sobre cuestiones de detalle pero aquí estamos hablando de una cuestión que no es teórica es práctica es decir es decisión es la toma de decisiones y ponerse en marcha los argumentos que nos dio el consejero en su día planteaban básicamente que en fin esto no se había hecho porque esperaban hacer una cosa

iniciativas que en forma de asociaciones están llevando a cabo actividades que desean transformarse en centros especiales de empleo para poder precisamente

y de tal manera que eso les asegure la pervivencia de su actividad pues no pueden hacerlo porque este tipo de entidades no pueden acudir por ejemplo al sepe

teniendo aquí esta competencia es aquí donde hay que hacerlo por lo tanto esas solicitudes a día de hoy quedan en vía muerta y cuando hablamos de políticas de empleo hay que ser más proactivo hay que ser más ágil más decidido y no

dejan las cosas como digo en vía muerta a la hora de llevar a cabo posibles acuerdos con los grupos parlamentarios hemos visto que

desdibuja todavía más la contestación del propio consejero porque dice bueno no en el dos mil catorce si es posible es decir por eso no hemos

no queremos que se haga en este ejercicio y queremos además que las solicitudes que se inscriban en tal registro puedan acceder a las ayudas

aparece que se van a dar treinta millónes de euros para los centros especiales de empleo claro para los existentes pero aquellos que quieren concurrir que tienen las condiciones y reúnen los requisitos

por lo tanto creemos que es de justicia que todas aquellas iniciativas que se pueden plasmar en actividades alrededor de un centro especial de empleo esas iniciativas sociales que surgen aquí y allá sean muchas o sean pocas tienen derecho efectivamente a disfrutar de esasayudas

con la señora llanos del partido popular hemos hecho una transacción perdón con euskal herria bildu agradezco a la señora zulaika su disposición al acuerdo pero en esa transacción no hemos juntado las pretensiones de uno y otro grupo sino que hemos incluido las del partido popular y

incluían en su enmienda pero no ha sido posible alcanzar una transacción con este grupo no obstante las razones de por qué

y en ese sentido la transacción lo que plantea es que en este periodo de sesiones como solicitaba el partido popular

este trabajo trabajo que por lo demás no supone mayor esfuerzo vengo acompañado de varios decretos de diferentes comunidades autónomas que habilitan los registros para los centros especiales de empleo y lo más que tienen son

esa decisión del consejo de gobierno no puede ampararse en

cuando la realización de este acto de gobierno es tan sencilla y además es para proteger a un colectivo del que siempre hablamos con especial veneración como colectivos a proteger

es que aquellas empresas aquellas solicitudes que se inscriban una vez que el gobierno habilite ese registro

acudir y concurrir a dichas ayudas porque a veces ocurre que se dan situaciones diabólicas es decir para cuando el gobierno decide hacer esto las solicitudes se inscriben

concurrir a ellas entendemos que esa dejación esa demora en la realización de trabajos que serían inmediatos no puede perjudicar a este tipo de entidades y a este tipo de personas que nutren estos centros especiales de empleo por lo tanto no hay mucho más que decir en este sentido

puramente resolutiva hemos alcanzado como digo un acuerdo con euskal herria bildu y espero que los demás grupos

apoyen esta transacción porque entendemos que recoge diferentes planteamientos

han traído a este debate aunque no haya sido posible la transacción pero entendemos que el espíritu que anima esta transacción
respuesta al objetivo que nos trae aquí y por otra parte creemos que es perfectamente atendible por el resto de grupos nada más y muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días de nuevo como ha dicho

señor itxaso estamos debatiendo hoy aquí una moción consecuencia de la interpelación que le hizo al señor consejero y relativa a la creación del marco administrativo de los centros especiales de empleo siempre desde este grupo hemos dicho que el empleo es un instrumento fundamental de integración lo es aún más si cabe en el caso de las personas con discapacidad la incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración

en estos momentos es cierto que el sector está preocupado porque

de desempleo e inactividad de las personas con discapacidad tan altas en euskadi

y es importante señalar que aumentar esas tasas sería importante valga la redundancia no solo para la integración de estas personas sino para la economía en general

obvia como ellos pusieron aquí de manifiesto cada euro que se invierte en este sector se reinvierte en seis en el sector público en cualquier caso y tal y como se puso de manifiesto

la tasa de desempleo de personas con discapacidad más baja de toda españa y la tasa de actividad de las personas con discapacidades junto con la de navarra está también a distancia de las del resto de españa y esos mejores datos se dan también en aquellos colectivos de personas con discapacidad que tiene una mayor dificultad en la inserción laboral como son las personas con discapacidad intelectual con parálisis cerebral personas con enfermedad mental

superiores al sesenta y cinco por ciento y la mayor razón de esta integración laboral de esas personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción la tenemos que realizar y como decía el señor itxaso en la importante labor que en euskadi ha desarrollado la iniciativa social

que precisamente lleve a aumentar estas posibilidades de empleo desde este grupo siempre será bien acogida como bien se ha dicho a la hora de hablar de empleo de las personas con discapacidad y de centros de empleo con discapacidad hay que empezar por hablar de la lismi esto es

de empleo pueden tener carácter público o privado con o sin ánimo de lucro y en la actualidad hay ochenta y siete centros especiales de empleo y solo el cinco por ciento de los centros son propiedad de empresas con ánimo de lucro el resto son de iniciativa social la normativa como usted también ha dicho

del ochenta y cinco de cuatro de diciembre y a tenor de lo dispuesto en su artículo siete se establece que para su creación es necesaria la obtención de la calificación por parte de la administración y su posterior

estatal o en su caso en el que corresponda de las administraciones autonómicas como

de euskadi a partir del uno de enero de dos mil once fecha en que entra en vigor la transferencia la calificación de estos centros pasa a ser competencia de nuestra comunidad autónoma concretamente

impulsarlo en la contestación por parte del consejero ya se puso de manifiesto que tenía que estudiarse si el procedimiento sería único para toda la comunidad autónoma o si la autorización concedida sería solo para uno de los territorios históricos que todo ello se estaba abordando y se estaba abordando conjuntamente con

permítame señor itxaso aunque siempre se lo diga que llama la atención que hubo casi dos años para poner en marcha este centro y si usted aquí ha puesto de manifiesto que son poco más de tres o cuatro artículos pues

durante en el periodo en el que ustedes estuvieron gobernando no sé si es que a pesar de que diga que no son más de dos o tres artículos existía una especial complejidad

si existe esa complejidad tal vez el plazo de dos meses no fuese lo suficientemente necesario en cualquier caso como le digo cualquier iniciativa que permita la integración

una cuestión de plazos que por lo visto señor itxaso no ha sido capaz de convencer al resto que en dos meses es posible hacerlo

llama la atención no sé es cierto que es un plazo que el partido popular mantenía que no sé si sigue manteniéndolo puesto que no ha firmado y entiendo que si no la ha firmado alguna diferencia habrá con la enmienda

se haga referencia a los agentes es cierto nosotros entendemos y el propio consejero dijo que este tema era un tema que se estaba hablando y que había que hablar con los agentes con los agentes entendiendo en un sentido amplio se especifica con los sindicatos y los agentes llama la atención que se haga referencia a los sindicatos y no se haga referencia ni siquiera

viene a recoger el noventa por ciento del empleo que hoy en día se está ofreciendo en euskadi con un modelo que ellos mismos reconocen que es y ha sido ejemplo besterik ez eskerrik asko

casi siempre es difícil saber por dónde empezar en este turno porque suele ser el fuego cruzado creo que empezaré por la señora llanos

alusiones del mismo modo no lo hicimos porque había una oposición que decía que iba a gobernar desde la misma y no planteó esta cuestión y el gobierno de entonces estaba afanado en tantas cosas que al no haber una oposición que

no lo hizo pero sí le diré que si hubiera sido de tal manera el gobierno anterior habría cumplido el mandato parlamentario vamos a ver

en cuanto a los plazos señor urkola efectivamente lo que nosotros le estamos demostrando es que no tenemos interés en apremiar y en hostigar al gobierno

lo que estamos tratando de poner de relieve es que hay solicitudes hay entidades que están llevando a cabo actividades desde una fórmula asociativa que quieren transformarse

no pueden hacerlo no pueden ser beneficiarios de las ayudas que para estos fines existen y dicen que están estudiando

con quiénes con los que ya están con los que ya están en la nómina de beneficiarios claro nosotros planteamos que entren otros agentes que no tienen interés

naturalmente pero es que si eso se queda en manos de los que ahora

qué es lo que ocurre que como los argumentos que se está dando para demorar este asunto personalmente me resultan

otra cosa es que usted pretenda que oír equivalga a aceptar los argumentos como validos y no esos argumentos me parecen a mí bastante evanescentes para digamos impedir una cosa que estamos solicitando y es que a estas solicitudes que existen para constituirse como centros especiales de empleo que están a la espera no se demoren no es hostigar al gobierno con plazos ni con nada se trata de que las ayudas de este ejercicio las que en el boletín oficial del país vasco hoy de publican por alcance de treinta millónes que no sé si serán

no sean solo para los que ya están sino para aquellos que quieren concurrir lealmente y cumpliendo esos requisitos esa es la razón

tenemos los mejores indicadores sobre lo qué es la inserción y sobre lo qué es la empleabilidad de estas personas

es por lo que nosotros no nos podemos andar tampoco por las ramas y ya digo no queremos un copiar y pegar pero lo que queremos poner de relieve es que este acto de gobierno no está sujeto precisamente a sesudas investigaciones y averiguaciones del tal y del cual no esto es más sencillo que todo eso es más sencillo que todo eso

es irse por las ramas lo que creemos y queremos es que en este ejercicio en este periodo de sesiones porque no estamos

efectivamente a ese régimen a estas ayudas y que puedan obtener la naturaleza jurídica que persiguen es por ellas por lo que venimos aquí no para hostigar al gobierno lo que pasa es que si el gobierno se llama a andanas tendremos que decirle para eso es nuestra labora de oposición impulso impulso impulso y esto lo que pedimos que se haga una cosa que realmente emplee un esfuerzo mínimo y que cualquier otra

salirse por la claraboya nada más

con su permiso señora presidenta desde el escaño porque voy a ser muy breve señor itxaso no es un argumento recurrente es que es así

otra serie de cuestiones es que la misma justificación se la puede dar el partido nacionalista a usted que si no lo han hecho hasta ahora es porque están afanados en otras cuestiones y eso de que es que

pero lo suyo es que lo haga el gobierno y que cualquier

pues hombre ya tiraremos de hemeroteca de este parlamento para ver cuántas

que no se trata de la creación de un registro sin más es verdad que el trabajo debe ir más allá pero el propio señor consejero

creo que ha transcurrido ya un año desde que tomó posesión este gobierno y creo que para un tema que es verdad que va más allá de la elaboración de un registro que no se trata de hacer un corta pega sino de hacer

amplio yo creo que el plazo que nosotros establecíamos es un plazo suficiente porque yo creo que se ha dicho aquí que no son importantes pero yo sí creo que las subvenciones y las ayudas son importantes porque en todos los momento

más en los momentos de dificultad económica como la actual y más cuando se está empezando una iniciativa nueva como sería el caso de la creación

hacerlo en un plazo que permita que las de nueva creación puedan acceder a las ayudas de este ejercicio me parece importante nada más muchas gracias eskerrik asko

entendemos que la opinión y la valoración de ehlabe primordial pero no solamente está elhabe hay otras asociaciones otros agentes implicado

lo hemos dejado en agentes está también elkartean el observatorio vasco de economía social esta reas entonces por no mencionar a todos porque seguramente

lo hemos dejado en agentes hori bakarrik esatea eskerrik asko zulaika andrea

el modelo mixto de gestión de itinerarios ocupaciones y de empleo buscando en realidad generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad

desde otras partes del estado que adoptaron otro modelo de desarrollo como una referencia en cuanto a los resultados de empleabilidad

esta historia del empleo especial en euskadi ha tenido el éxito que ha tenido

fuerte base asociativa de las iniciativas que promovieron esas primeras iniciativas empresariales y que hoy siguen conformando señor itxaso esta base asociativa es la que usted entiende que tiene intereses crematorios déjeme que discrepe

un tema de una carrera de plazos yo estoy seguro de que ante la tentación de presentar una enmienda a la totalidad pidiendo un mes usted hubiese retirado la suya

porque no es la primera vez que con ciertos aspectos que el gobierno establece que los va a hacer y encima dando prueba y dando fe de que

antoja que es uno de esos que yo sepa el treinta y uno de diciembre del dos mil diez que es cuando se produce la transferencia y aquí

se ha comentado en el gobierno vasco no sé si gobernaba pero por lo menos estaba el partido socialista

justo quienes transcurridos veinticuatro meses no fueron capaces de articular un simple registro de esa comparativa de las normativas de las comunidades del estado

le agradezco su confianza en la capacidad del partido nacionalista pero también es verdad que

pero lo que sí es cierto es que en lanbide se ha tenido que poner orden en ciertos aspectos no solamente en cuanto

de aspectos que venían y también y cuando se habla de que las nuevas

con que las actuales las existentes deberían de tenerlas y deberían de tenerlas actualizadas no con plazos de gestación que venían de nueve meses en ciertos periodos por lo tanto

poco más que decir en ese aspecto

del año dos mil catorce que solicitó el consejero aburto que ha demostrado con

actualizando los pagos a día y no a los nueve meses está cumpliendo que se le de